batzuk badaude behintzat gai hau jarraitzeko el partido popular presentó esta iniciativa en concreto tengo que decir que esta iniciativa fue presentada ya al finalizar la legislatura anterior porque habíamos

una deficiencia en el funcionamiento del sistema de protección

mejorada que tenía que ver con la presentación de las solicitudes tal y como establece el artículo cincuenta y nueve punto uno de la ley cuatro barra dos mil once de veinticuatro de noviembre de modificación de la ley de garantía de ingresos y

que todos recordaremos que esta ley modifica a su vez la ley dieciocho barra dos mil ocho de veintitrés de diciembre para la garantía de ingresos y para la inclusión social digo que en este artículo ya de la nueva ley se dice lo siguiente el acceso a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda han

como prestaciones económicas de derecho se realizará previa solicitud de la persona interesada dirigida al gobierno vasco y presentada a la oficina de lanbide servicio vasco de empleo que corresponda al municipio que tenga su empadronamiento y residencia efectiva

a la persona solicitante cuanto información y orientación se haga necesaria para la tramitación

en las diferentes oficinas de lanbide distribuidas por toda la comunidad autónoma en los tres territorios

al margen del municipio en el que se tenga el empadronamiento y residencia efectiva dificultaba a las personas solicitantes

evidente por ejemplo en álava en la zona de la rioja alavesa

al municipio en donde estaba erradicada la correspondiente oficina

dificultaba a nuestro entender y así nos ha llegado además a las personas solicitantes realizar los trámites correspondientes a la solicitud de estas prestaciones

oficina nosotros entendemos que había que facilitar

modificaciones pertinentes para que los ayuntamientos también

estas solicitudes ese es el objeto de esta proposición no de ley también todos recordaremos que con la última modificación

y resolución de estas prestaciones económicas la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda y también lo relativo a los convenios de inclusión

la gestión de estas prestaciones para buscar una mayor

junto con la transferencia de las políticas activas de empleo había una oportunidad muy clara de conectar y vincular las prestaciones económicas al empleo vuelvo a repetir esta idea que ha sido reiterada por este grupo en ya muchas ocasiones en ocasiones además que hemos tenido oportunidad de tener debates de estas características que

salgan del sistema de protección y que las personas estén en este sistema en el sistema de protección y reciban ayudas sociales durante el tiempo que lo necesiten pero a intentar que no se cronifiquen en el sistema y el objetivo último tiene que ser la

no ha sido posible llegar a un acuerdo en la enmienda de transacción que han firmado el partido socialista y el partido nacionalista vasco por alguna diferencia que voy a tratar de explicar en algún punto en concreto sí que entendemos

planteábamos en el primer punto cuando se dice que se insta al gobierno vasco a seguir mejorando el funcionamiento de lanbide la verdad es que también hay que decir que hay muchas cosas que mejorar

y en su caso promover los acuerdos pertinentes con

creemos que de alguna forma puede estar en esta redacción incluida

intención de subsanar como decía esa

de protección al presentar las solicitudes y tener solo que hacerlo las oficinas en los municipios donde están radicadas las oficinas de lanbide en el segundo punto

y sí que nos ha chocado el tercer puntol que insta al gobierno vasco a promover los acuerdos necesarios

previos a su incorporación laboral para personas que se encuentren en situación de exclusión social

no tenía mucho que ver con la iniciativa en concreto que perseguía como decía el fin

referencia abrir la posibilidad de que en los ayuntamientos también se puedan recepcionar

solicitudes porque entendemos que el objetivo de la ley como decía anteriormente es vincular las prestaciones económicas con la empleabilidad

ya hay una oportunidad de vincular las ayudas sociales a la formación y al empleo

la ley en el artículo se dice en el artículo sesenta y cinco se dice expresamente que a los efectos de la presente ley los convenios de inclusión se definirán

no entendemos el sentido de este párrafo aquí porque no aporta

artículo correspondiente que hace referencia a los convenios de inclusión se dice que son acciones especificas de carácter social y laboral necesarios para prevenir riesgos o situaciones de exclusión hay una referencia expresa en este artículo

de acciones y hay un punto expresamente en el que se habla de acciones necesarias para facilitar la inclusión

por otra parte en la ley doce barra dos mil ocho de cinco de febrero de los servicios sociales donde se articula el sistema vasco de servicios sociales

y así se hace referencia a los servicios sociales a los servicios sociales municipales a los servicios sociales de base a servicios forales y a servicios

la inclusión de este punto porque ya la ley está

la atención social a estas personas la atención social a los diferentes servicios tal y como contempla

en definitiva sí que mantendremos nuestra enmienda por entender que

pero no nos vamos a oponer a la enmienda de transacción acordada por el partido socialista y el partido nacionalista vasco eso sí pediremos la votación por puntos
y en su caso votaremos los dos primeros puntos en el último por las razones que acabo de explicar nos atendremos nada más muchas gracias eskerrik asko

buenas tardes señorías intervengo en este parlamento en representación del grupo socialistas vascos con el fin de debatir la proposición no de ley presentada por el grupo popular vasco

y así como defender la enmienda transaccional acordada entre mi grupo parlamentario y el grupo nacionalistas vascos

todos sabemos que el objetivo fundamental de la reforma que supuso tanto la ley dieciocho barra dos mil ocho como la reforma misma recogida en la ley cuatro barra dos mil once era

una reforma que no había podido plantearse sin la transferencia desde luego de las políticas activas

la transformación de una política de protección social basada en el empleo y no en el subsidio era un reto que se puede afrontar desde dos perspectivas o dos ideologías

como antes lo fueron los servicios sanitarios y los educativos porque no hay una línea divisoria entre personas que se acercan a los servicios de empleo y otras que se hayan excluidos de los mismos y lanbide servicio público de empleo tiene un carácter inclusivo ocupándose de los

de los que son menos atendiendo a quienes cobran desempleo y quienes cobran la renta de garantías de ingresos gestionando por primera vez en el estado

porque los ciudadanos que se encuentran bajo el sistema de protección social no solo deben recibir prestaciones sino oportunidades esta reforma se basaba en la situación de centralidad del empleo como elemento de inclusión y la convicción de que como tal debe constituirse

orientación a la inclusión un principio que remite a derechos y responsabilidades de los perceptores de prestaciones y un sistema que debe ser transparente justo

para el empleo la inclusión laboral ha sido una asignatura pendiente hasta la fecha en el sistema de renta de garantías de ingresos y a pesar del esfuerzo y dedicación que se ha efectuado desde los servicios sociales este cambio supuso

que euskadi entrara en la vanguardia de la innovación de las políticas sociales y de empleo porque no se trata de hacer una política social basada en la mera percepción de una prestación y porque en ese caso por mucha cantidad que abonásemos si no va unida a una política de empleo no conseguiríamos mejorar en lo que se refiere a las políticas de empleo y ese fue un salto cualitativo que dio la ley

sobre el pensamiento de que las políticas activas bien diseñadas son útiles para reducir los períodos de paro de hecho estas políticas son la tercera pata junto con el coste de despido bajos o prestaciones de desempleo generosas de la llamada flexiseguridad que practican países como dinamarca como hemos ya dicho esta mañana

tres barra dos mil doce de seis de julio y digo que ha querido introducir porque

que ha avanzado tras la reforma hacia un modelo de flexiseguridad sobre todo

en la reducción de costes de despido o incremento de flexibilidad interna pero apenas nada

agravado con que la financiación de estas últimas se ha hecho más difícil en la nueva filosofía del sistema la centralidad está en la activación social y el principio posibilitar la formación y el empleo y la igualdad de oportunidades en el marco laboral ordinario

que se encuentre en situación de desempleo o exclusión social

es importante tener una ventanilla única donde

se pueda ver cuál es su situación familiar y ver también problemas que pueden tener

la gestión de las aes del sistema de garantías de ingresos correspondiéndole a los ayuntamientos tenemos que dar una confianza en el sistema para que el sistema

que reciben ayudas sociales son empleables es por ello importante rescatar a esas personas para el empleo e incorporarlas al mercado de trabajo

hacer esto es necesario estar con esas personas y poder realizar un estudio de su situación quiero dejar muy claro que mi grupo está completamente convencido de que hay que mantener el sistema vasco de garantías de ingresos e inclusión social aunque haya que mejorar y agilizar el funcionamiento de lanbide

y la prestación complementaria de vivienda y en su caso promover los acuerdos pertinentes con instituciones o entidades que faciliten el proceso hay que dignificar

la ley de garantía de ingresos ofrece evidenciando e informando a la ciudadanía de que casi uno de cada dos de los perceptores lo son de rentas complementarias que son gente que ya trabaja o son pensionistas

es procurar una condición de vida dignas para todos los vascos y vascas euskadi ha sido un referente

si no lo desarrollamos y lo reforzamos estaremos más cerca de desandar el camino andado que de seguir siendo líderes en esta materia la sociedad vasca debe sentirse orgullosa del sistema de protección social alcanzado

sistema lo hemos construido aquí en este parlamento y a nosotros los políticos vascos nos corresponde defender este sistema que garantiza de forma incuestionable

hacemos una mala política cuando habiendo alcanzado acuerdos importantes sobre la bondad del sistema de protección social que supone un enorme esfuerzo para las arcas públicas empezamos a cambiar constantemente el sistema sin dejar que se consolide el desarrollo y ejecución de una forma adecuada

con anterioridad a la reforma los servicios sociales de base estaban desbordados por las tramitaciones administrativas de prestaciones pero esto ha cambiado

efectuada esa reforma liberó a amabas administraciones de la gestión de rentas de garantías de ingresos y la prestación complementaria de vivienda nos emplaza a seguir trabajando en la inclusión social en buscar espacios de cooperación existentes entre ambos ámbitos porque una cosa no impide la otra por tanto termino defendiendo lo recogido en la enmienda de transacción

a seguir tomando todas las medidas necesarias para seguir mejorando en el modelo de orientación de lanbide basado en la atención personalizada e individualizada de las personas usuarias de los servicios de empleo

para la consecución de los objetivos de empleabilidad de las personas desempleadas y de calidad y mantenimiento del empleo de las personas

promover los acuerdos necesarios con el resto de instituciones

para personas que se encuentren en situación de exclusión social y por último promover los acuerdos pertinentes con instituciones o entidades
la entrada administrativa de documentos relativas a tales prestaciones de acuerdo con la legislación vigente nada más y muchas gracias eskerrik asko

de totalidad que proponía que este parlamento inste al gobierno vasco a que refuerce la estructura

retrasos en la tramitación de las solicitudes de renta de garantía de ingresos y en la prestación complementaria de vivienda lo cierto es que en todo este tiempo no ha habido ningún grupo que se haya acercado

firmar ningún tipo de transacción con lo cual lo que nos queda

a favor lógicamente de nuestra enmienda de totalidad en nuestra opinión las instituciones tienen que prestar los mejores servicios con la mayor eficacia y con los costes adecuados en estos tiempos de crisis tienen que tener mucho más cuidado tienen que ser mucho más cuidadosos

que es de todos los ciudadanos por eso nosotros proponemos que sea lanbide quien preste el servicio de la renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda

para prestarlo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia y se resuelvan de una vez los problemas de retrasos y colapsos que hemos vivido en etapas anteriores los solicitantes de estas prestaciones son personas que efectivamente lo están pasando mal son las personas que más están sufriendo la situación de crisis

personas que pueden estar en riesgo de exclusión

ser muy eficaces y diligentes a la hora de tramitar esas solicitudes y dar una respuesta a cada uno de las personas que plantean sus demandas no creemos que en nada vaya a mejorar porque en cada ayuntamiento

otra oficina o habilitemos nuevas ventanillas donde se recojan las solicitudes lo único que estaremos haciendo es duplicar servicios y gastar más dinero

la preocupación del grupo populares vascos cuando valora el perjuicio que supone desplazarse unos kilómetros para quien tenga que tramitar

complementaria de vivienda pero nunca vamos a conseguir que todos los servicios los tengamos a la puerta de casa porque eso además no sería en absoluto eficiente

el de eficacia en la prestación del servicio y comodidad para los demandantes de servicios

en nuestra opinión la tiene que jugar el gobierno y será el gobierno quien deberá decidir o tendrá que valorar cuándo y dónde abren nuevas oficinas de lanbide porque haya demanda suficiente para justificar una nueva oficina

realicen esa labor por eso y en conclusión votaremos en contra de la iniciativa original

hay que tener en cuenta que en este momento debido a la precariedad laboral y al desempleo cada vez son más las personas que tienen necesidad

a solicitar prestaciones económicas y que es precisamente en este momento cuando la gestión de lanbide

diferentes colectivos sociales y al igual que dichos colectivos sociales defendemos el derecho a unos servicios sociales dignos y a una gestión de calidad

nolabait planteatzen dena da seguir mejorando en el funcionamiento seguir tomando medidas para mejorar promover acuerdos con el resto de instituciones eta

guk ulertzen genuen proposamena beste maila batean se proponía facilitar a muchas personas el poder entregar las solicitudes y los papeles

pero también en los ayuntamientos y por eso proponíamos como he dicho anteriormente esos dos puntos que

inicial hablar en este momento de todas las personas y del trabajo sobre el tema de la empleabilidad que tiene que hacer lanbide cuando no hay empleo nos parece que posiblemente no es el debate del día de hoy

que a la gente se le favorezca y se le pongan los medios para que

difícil acceder para poder entregar incluso unos papeles

esa es nuestra propuesta y nuestra aportación a este debate

las leyes no se pueden cambiar una y otra vez dependiendo del partido que esté gobernando máxime cuando hace solo un año largo que entró en vigor por otro lado

que la modificación fue impulsada y aprobada por ustedes y por el partido socialista por lo tanto

con el funcionamiento de lanbide como ha dicho en varias ocasiones el consejero aburto

hay que descongestionarlo de tareas meramente administrativas supongo que todos los grupos compartirán

para cobrar el complemento de las mismas para que lanbide pueda dedicarse a dar un servicio personalizado y de calidad a las personas demandantes de empleo que se han de promover los acuerdos pertinentes con instituciones o entidades que faciliten la entrada administrativa en el sistema de gestión de prestaciones el departamento deberá articular de la forma que estime más eficaz acuerdos con otras instituciones o entidades que facilitan la entrada en el sistema tanto de las solicitudes como de otro tipo de cosas que puedan dejarse

con otras instituciones o entidades porque lo que tenemos muy claro es que el funcionamiento de lanbide

ágil eficaz y cercano posible para lo cual es imprescindible la implicación del resto de instituciones y entidades todas

así mismo entendemos que con el mismo objetivo de mejorar el funcionamiento de lanbide es importante lograr acuerdos entre instituciones que faciliten procesos de incorporación social

porque entendemos que hay personas que por las situaciones las circunstancias que sean

conseguir su inserción social antes que la laboral por lo tanto entendemos que de esa forma también es una forma de

lanbide por lo tanto hemos firmado una enmienda transaccional que recoge las ideas principales que hemos expuesto a lo largo de la intervención en resumen

y de la pcv promoviendo los acuerdos que se estimen pertinentes con otras instituciones o entidades que hagan más

la tramitación de las citadas prestaciones el gobierno seguirá tomando las medidas necesarias para mejorar el modelo de orientación de lanbide de modo que mediante una atención personalizada e individualizada a las personas usuarias consiga mejorar la empleabilidad

por último a aquellas personas que por diversas circunstancias se hallan en riesgo de exclusión social

andrea eskerrik asko zure baimenarekin eserlekutik bueno a la señora sánchez le diría que coincidimos

que ha manifestado hoy en esta cámara no en vano la pasada legislatura llevamos entre el partido popular y el partido socialista a un acuerdo muy importante

en los requisitos de acceso a estas prestaciones recordemos que establecimos

o un año y cinco de vida laboral también se modificaron las revisiones que se hicieron más periódicas en relación a estas prestaciones y también se modificó

en esa coincidencia del discurso que hoy ha mantenido usted en esta cámara sí que tengo que decir que anteriormente en la legislatura anterior el partido socialista no tuvo ese

la hemeroteca y la gestión hay que mejorarla decía

para ello al señor maneiro sí le pediría que creo que se ha ido o no le veo se ha ido le diría se lo voy a decir por lo menos para que conste en acta que no falte a la verdad no sé si había muchos testigos cuando

a la tarde creo que estábamos solos me apena que luego han entrado algunas personas como el lehendakari y el consejero pero le he dicho expresamente hay posibilidades y se lo he dicho a lo largo de la mañana de poder llegar a un acuerdo

tema teníamos discursos radicalmente diferentes y hablaba él de que

yo creo que el señor maneiro a veces mantiene un discurso bastante simplista y bastante demagógico porque no hablamos en absoluto

los ayuntamientos que podrían recepcionar esta solicitudes o la

administrativa relacionada con este tipo de prestaciones

la realidad del territorio histórico de álava es parlamentario por álava pero no vive en álava pero en la zona concreta de la rioja alavesa en donde hay una oficina en oyón

personas mayores que tienen que solicitar complementos de pensiones y por ejemplo en la rioja alavesa se tienen que trasladar a la correspondiente oficina de lanbide que está radica

perjuicios y a la señora

usted recordará porque tuvimos ocasión de tener este debate en la legislatura pasada que este grupo ya presentó en la modificación de la ley la enmienda correspondiente por lo que hemos mantenido una coherencia presentamos la iniciativa

que había que hacer cambios en el sentido de la iniciativa presentada y yo en cualquier caso

brevemente señalaré una serie de cosas el sistema de renta de garantías de ingresos que mantenemos con la reforma

como no lo hace ninguna prestación económica dentro del estado y además la vincula a la activación para el empleo aunque desde mil novecientos noventa la ley de ingresos mínimos de inserción se hablaba ya de la necesidad de esa centralidad fundamental de la inclusión social no habíamos sido capaces de desarrollarlo

con los servicios sociales teniendo los mismos escasa capacidad para poder vincular el empleo con el trabajo ahora

de lanbide al igual que pasan el resto de personas que solicitan un trabajo y por tanto están dispuestos para ser activados en el momento

o a las personas que lo demandan y a su vez las ayudas de emergencias social son llevadas a los ayuntamientos yo creo que ese es un buen sistema hemos creado un buen sistema y no necesitamos cambiarlo a través de acuerdo de colaboración con servicios sociales municipales o protocolos interinstitucionales

de aquellos casos de personas que durante el proceso de activación laboral individualizado se considere que puede ser conveniente derivarlos para servicios municipales de base y en los supuestos en los que se pueda marcar dentro de los mismos pero para ello no necesitamos tener que modificar la redacción existente en estos momentos en la normativa que la regula en esta materia y yo también

por el señor maneiro porque no se puede llevar a cada municipio la posibilidad de poder gestionar absolutamente todo lo que necesito

el pedir prestaciones de incapacidad y por qué no el desempleo y por qué en otras cosas no porque el sistema está regulado para que distintos organismos lleven las cosas que tienen que llevar y se tienen que presentar donde se tienen que presentar y es imposible tener oficinas para poder

a pie de su municipio porque eso es imposible de gestionar

entre los servicios municipales y lanbide siempre con el propósito claro está de lograr una activación laboral y social de los perceptores de una prestación económica esta colaboración servirá para eliminar o reducir también posibles duplicidades

así como para evitar que nadie pueda quedar sin atención a medio camino

entre ambos puntos sigamos trabajando por tanto

del sistema sin dar bandazos ni cambiar las reglas de juego a mitad del partido

no desordenemos lo que está ordenado y acabamos de ordenarlo como bien decía

hace un año es por ello por lo que defiendo la enmienda transaccional

ha firmado con el grupo nacionalistas vascos y no tengo ningún inconveniente en el que los tres puntos recogidos dentro de la misma puedan ser votados

lo que sí quiero dejar claro y manifestar es que no quede la menor duda que el departamento va a hacer y está haciendo todo lo posible

entidades para agilizar y mejorar en funcionamiento de lanbide que desde un principio hemos dicho que

como a todos nos gustaría por lo tanto va a hacer y está haciendo ya

y aunque sé que hay muchísimo por hacer eta argi daukagu

perdón señora presidenta

muchas gracias señora presidenta señor balantzategi nos viene usted a decir aquí hoy

y yo le tengo que decir que las cajas de ahorro

cuando usted nos habla de banqueros referidos a kutxabank supongo que se les está llamando banqueros a las cajas de ahorros a la bbk a la kutxa y la vital que son los dueño de kutxabank

ha venido usted a traer aquí un debate serio pues hablemos en serio cuando usted critica a la banca y a los banqueros estará criticando a las cajas de ahorros

al cien por ciento cuando usted nos dice que están de acuerdo con el objeto social de kutxabank y lo que están pidiendo es que se cumplan sus principios

usted no está planteando eso en su propuesta inicial

finalidad de kutxabank es la obra social usted sabe que eso es falso

esa es la finalidad de las cajas de ahorros que son los banqueros y que son los dueños del banco la finalidad del banco no es la obra social la finalidad del banco es ganar el suficiente dinero

puedan destinarlo a la obra social porque si el banco no gana dinero hay cero obra social y esto lo sabe usted

y lo sabemos todos por lo tanto lo de la seriedad usted nos dice que bildu lo que plantea es que todo siga igual porque hasta ahora por lo visto se hacía muy bien pues a lo mejor bildu nos tiene que explicar

los mismos en las tres cajas y en kutxabank

son los ciudadanos que no son los bancos y que los beneficios de los banqueros son los responsables del recorte pues es que en este caso es lo contrario

más dinero se podrá destinar a la obra social de las cajas de ahorros y esto está así en los estatutos y en todos los acuerdos las cajas de ahorros se financian de los beneficios de kutxabank pero es que

que lo sabemos todos hace tiempo que tengamos que venir aquí a decir que es que la obra social

lo sabemos y usted que nos plantea su primera propuesta que se asegure que kutxabank garantizará las partidas necesarias

la acción social de las diferentes cajas kutxabank tiene cero euros

destinadas a la obra social de las cajas cero siempre ha tenido cero lo que tiene es beneficios que se adjudican a los

y kutxabank ni va a tener ni tendrá

que le repito existen a día de hoy existen y usted nos dice no y que se mantenga

si el banco gana menos dinero que otros años tiene menos beneficios y usted lo que quiere es que los accionistas los banqueros repartan más dinero o el mismo que otros años anteriores aquí caben pocas opciones si el beneficio cae

yo no sé si usted nos está proponiendo aquí que se recorte el sueldo de los empleados de kutxabank para que las cajas de ahorros dispongan de más dinero para poder repartirlo en la obra social porque a usted también le parece mal que

porque también nos dice que hay algunos que llaman virtud a tener beneficios y usted está en contra por lo visto de que el banco tenga beneficios

y este es el debate serio que usted nos ha traído hoy aquí en esta materia

tendría que estar ser el primero a quien defender el negocio bancario de kutxabank y que kutxabank tenga cada año más beneficios para que las cajas de ahorros puedan hacer cada año más obras sociales eso siendo un poco coherente

malísimos del mundo mundial y usted está en contra del negocio bancario y por lo tanto el banco no tiene que ganar dinero

de dónde pretende que salga el dinero para financiar la obra social desde luego yo le voy a escuchar muy atentamente en el siguiente turno

bildu nos propone hoy una proposición no de ley para que este parlamento se posicione sobre los recursos que

destinan a la obra social los socialistas hemos presentado a su propuesta

parte de la propuesta que ustedes hacen sobre todo la que se refiere a la cantidad

a la obra social que coincide con el planteamiento de que sean los mismos que en el año dos mil doce y hemos añadido dos cosas más hemos hecho un relato de prioridades en el gasto sobre qué aspectos

los recursos de la obra social y también hemos incluido el sostenimiento del programa vitalquiler como acción concreta de obra social ya que ha coincidido la tramitación de esta pnl con un debate abierto

financiera en relación con esta parte de la obra social de atender con recursos a personas jóvenes con necesidades de vivienda y con

de esos jóvenes para poder tener esa autonomía el debate aunque sea mediante esta

es evidente que tiene bastante más trascendencia de la que podamos darle hoy aquí que estamos viendo un aspecto parcial de la deriva de las cajas pero que efectivamente desde un punto de vista social nos tiene que preocupar

diferentes efectivamente estamos en un tiempo de transición las cajas vascas y su obra social se limitan y se reducen en su acción y una transición que exige por lo tanto a tenor de lo que está ocurriendo que recordemos quién fundó las cajas quién las ha gestionado y qué espacio público han ocupado porque las cajas

en cualquier sitio sino que nacieron con una voluntad

de tener una función social y por lo tanto esto es lo que durante muchísimos años

el sistema bancario ha empezado a desmantelarse y a tomar otro rumbo a tomar otra dirección es evidente

la política de bancos y cajas buscan la desaparición de las cajas y buscan su función social

esta es la problemática política a la que nos enfrentamos en relación con las cajas y en relación con los bancos se persigue

del sistema financiero y desde luego hasta hoy hay que reconocer que desde hace unos años cuando se ha iniciado esta política

han tenido el poder suficiente para poder ir avanzando en ese rumbo los socialistas

mirando un poco hacia atrás hemos aceptado y hemos acordado además algunas de las reformas de las cajas

inalterable y que hay cosas que hay que actualizar y que hay que modificar por ejemplo nosotros estábamos de acuerdo con que las cajas

que tenían que tener una dimensión diferente que se tenían que reforzar mediante

que había que hacerlas crecer que había que buscar que además todo eso se pudiera hacer combinando en el caso de las cajas vascas con su

y con el control público y la dirección pública con que se pudiera desde la política atender esa dirección también y ese control público

pudiera servir para la función primordial de las cajas esa obra social esta es la política que nosotros hemos venido defendiendo porque además la obra social de las cajas

a la política social de las instituciones por lo tanto eso

a las cajas una posición dentro de la ciudadanía una querencia

fomentando en la medida en que realmente ese sea el rumbo de estas cajas y no otro con el que podemos estar diametralmente

en estos momentos la política de cajas está tomando un rumbo la gestión se está alejando del sentido social por el que fueron concebidas y las decisiones importantes se imponen desde otros lugares reguladores y cada vez hay menos capacidad de decisión en relación con lo que son las cajas y para lo que sirven las cajas los consejos y las asambleas

ven muy limitada su capacidad de decisión y todo se está preparando además para que el capital privado termine apareciendo en las cajas y desplazando definitivamente en la medida en que pueda aparecer esa gestión

una realidad es un problema para quien crea en las cajas y para quien crea en la función social de las cajas obviamente no es un problema para quien crea que las cajas son

de la historia y que tienen que atender al negocio bancario como unos bancos más quienes participen de esta segunda opción lógicamente

pero quienes no lo hacemos así tenemos que decir que esta deriva necesita

y es hoy aquí lo que queremos expresar los socialistas esa reacción los socialistas queremos reclamar políticamente

de otros lugares porque kutxabank opera ya en más sitios que en el país vasco

es que las cajas puedan seguir defendiendo esa función social y para eso es bueno que la propia sociedad sepa

al contenido de cómo se aborda hoy el funcionamiento de las cajas

y la enmienda que hemos planteado apunta en esa dirección a que no nos tenemos por qué conformar con el rumbo que han adquirido últimamente sino que

lo expresamos con un contenido político que buscamos y que perseguimos la pregunta que nos tendríamos que hacer es

paulatinamente su obra social para qué las queremos qué necesidad tenemos yo creo que los impositores de las tres cajas vascas

que hemos tenido siempre en esas entidades financieras está fundamentalmente motivada por su

no creo que nadie sea o casi nadie sea impositor de una caja

productos financieros depósitos intereses bancarios ha ofrecido productos que sean más competitivos en muchos casos que los que ofrecen los bancos más bien al contrario más bien no ha habido salvo en pocas cosas competitivamente demasiado atractivo muchas veces por las cajas en muchos de sus productos sin embargo

a una función social con nuestros ahorros o con nuestra forma de participar dentro de ese tipo de entidades financieras pero es cierto que esto se está dilapidando y por lo tanto nosotros también queremos contribuir a elevar la voz a llamar la atención a trabajar por corregir este

habíamos presentado una enmienda de totalidad una enmienda que plantea que los recursos que se destinen

sean iguales en cantidad al año dos mil trece que la prioridad del gasto se centre en el empleo en los jóvenes en la tercera edad que se mantengan los programas de atención socio educativa y socio sanitaria y finalmente como también he señalado se mantenga ese programa de vitalquiler no solo para los que ya existen sino para aquellos que puedan tener por sus características acceso

de vivienda para los jóvenes esta es la posición política nuestra entendiendo que este parlamento no tiene que

como si fuera el consejo de ninguna caja o de ningún banco sino que tiene que actuar guiado fundamentalmente por el criterio político

es que queremos rescatar esa función social que se está perdiendo y ese interés y control público de las cajas que se está perdiendo muchas gracias

a las y los impositores vascos su representación en los órganos de gobierno de las cajas vascas eta beste erreplika batean

a las y los ciudadanos vascos a las y los impositores vascos a los que ponen su dinero en las cajas devuelvan su representación en los órganos del gobierno de las cajas vascas zure koalizioko kide diren alderdi politiko bik

relatado su posicionamiento histórico señor prieto

en relación con las cajas que había que hacerlas crecer también permítame

que cuando en su momento se planteó la fusión a tres primero y fracasó se planteó la fusión a dos y fracasó no fuimos nosotros no fue

algunos de los partidos que están aquí tendrán algo que decir nosotros sí hemos hecho mucho

realmente por las cajas para que sea unas cajas fuertes y fortalecer esas

resulta necesaria la contextualización de los presupuestos de la obra social en

vulnerabilidad económica de la obra social depende económicamente como aquí se ha dicho en reiteradas ocasiones de los rendimientos de una actividad bancaria

en función de los ciclos económicos sabemos todos a estas alturasde la profunda crisis que ha ralentizado la actividad económica y también

mayores dotaciones en los últimos años un análisis de la estructura de gasto social del gasto de la obra social de las cajas debe partir

había registrado los últimos años las mayores dotaciones de su historia consecuencia del incremento de beneficios generado por esa actividad financiera

dotaciones extraordinarias se desarrollaron proyectos extraordinarios por ejemplo inversiones en infraestructuras por poner un ejemplo

supuso una inversión equivalente al ochenta por ciento de la dotación de la obra social en el año dos mil uno inversiones que ahora podemos disfrutar prudencia en la gestión

expansiva está permitiendo que en época de contracción

a un entorno de menores recursos disponibles un entorno que afecta a todas las instituciones públicas y privadas como bien sabemos en esta cámara tal vez no haya dinero para inversiones pero hay para programa zuk

hainbat programarako para las que usted ha mencionado también señor prieto

para los programas socio sanitarios para programas de empleo para programas de jóvenes para atención residencia para mayores para los centros para mayores

a la discapacidad hay para todos los programas en cuarto lugar alianzas estratégicas al objeto de ser más

con distintas entidades públicas y privadas por ejemplo para la gestión compartida de centros igual que el resto de instituciones públicas y privadas

para ello al igual que el resto de instituciones públicas y privadas deberán ajustar al máximo partidas de gasto corriente rediseñar los modelos de intervención reajustar las partidas de los convenios de colaboración tendrán que hacer muchos ajustes también al igual que el resto de instituciones públicas y privadas

si la gestión de la obra social por parte de las cajas no fuera eficiente y prudente la pervivencia de la obra social tal vez

muy bien por tanto debemos dejar trabajar a kutxabank y a las cajas debemos dejar trabajar a quienes han demostrado que lo hacen bien porque

que ha salido esta semana de carlos etxeberri publicada en la prensa cogiendo la idea no se puede estar continuamente

la cuerda se rompe a nosotros nos gustaría saber zein den isasi jauna arrazoia zuen

gracias presidenta voy a ser creo que bastante breve nosotros hemos defendido

fundación como partido político la despolitización y la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros hemos defendido que los juegos políticos y los intereses de los partidos políticos no manoseen las decisiones de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros que no traten de imponer sus deseos y sus intereses y en definitiva que no

ha venido ocurriendo también también en euskadi en los últimos tiempos la politización de las cajas de ahorros españolas es un hecho

en los últimos tiempos esta politización está en la raíz de los problemas que estas entidades han tenido con el coste que ha supuesto para el conjunto de los ciudadanos y para el erario público y en nuestra opinión se trata se trataba de que los gestores de las cajas sean realmente profesionales y sean ellos los que tomen y gestionen

no se ha producido en los últimos tiempos aquí se ha hablado de la función social de las cajas de ahorros y hay quien sigue defendiendo

por las diferentes cajas de ahorros pero lo cierto es que las cajas de ahorros politizadas contribuyeron a financiar la última fase de la burbuja inmobiliaria

concedieron créditos arriesgados a empresarios afines al poder político

condonaron también deudas a los partidos políticos por intereses lógicamente partidarios por todo ello nosotros defendimos y pusimos mucho énfasis en ello la profesionalización de las cajas y su despolitización y así

casi siempre en solitario y lo defendimos también en este parlamento en varias ocasiones y lo defendimos también en este parlamento cuando se debatió se votó y se aprobó la

es cierto que las cajas de ahorros vascas han estado mejor gestionadas pero este hecho no debería implicar que

absolutamente fundamental defender y alcanzar esos objetivos y principios de máxima profesionalización y máxima despolitización

no votaremos a favor de ninguna de las propuestas creo que este parlamento no está para ello creo que este parlamento no está para decir a las cajas y a los bancos lo que deben hacer

tal como aquí se ha dicho se trata de que kutxabank funcione de la mejor manera posible obtenga los máximos beneficios posibles y tenga

puedan disponer de más dinero y puedan destinar más dinero también a la obra social pero en todo caso no hace falta que nosotros se lo recordemos y nosotros no se lo vamos a recordar

si me he equivocado a la hora citar antes su segundo apellido y desde luego no pretendo darle lecciones de nada

después de escucharle usted termina diciendo las

izquierdas o que se autodenominan izquierdas de que es que los demás estamos a favor del ladrillo

porque nos gusta que nos roben porque somos idiotas sí sí es que este es el planteamiento

nos encanta que nos roben estamos a favor de que el dinero se lo lleven no sé quién y además que nos lo roben y estamos contentos este es un mensaje me parece bien pero en fin

si el dueño es público bankia hoy es público porque el dueño es público kutxabank hoy qué es público o privado para usted qué es público o privado

pues se lo voy a decir es público pero de mentiras porque como europa prohibía hace mucho tiempo que las cajas fueran públicas sabe usted y lo sabemos todos las chapuzas que se han hecho para conformar

que las entidades fundadoras o las administraciones tengan menos del cincuenta por ciento para que cuelen en europa pero quién manda evidentemente las administraciones públicas

entonces de qué estamos hablando estamos hablando de un banco que está haciendo y defendiendo el ladrillo

no eran ustedes partidarios de que no se desahuciara a nadie si no se pagaba

a los insolventes de los créditos que no solo tienen que ser hipotecarios qué actuaciones tiene que tener kutxabank

hay menos dinero en el beneficio menos a repartir

le llama banca ética pública y solidaria no digo es eso

pues parece que estamos de acuerdo y parece que es lo que practica kutxabank entonces a qué viene su discurso y su planteamiento como si eso no fuera así si la caída de los beneficios es parte es por eso

y lo sabe usted y lo sabemos todos por qué nos plantea eso usted nos dice

más de quinientos millónes para fondos para cumplir los ratios de solvencia pero qué pretende usted que por insolvente lo intervenga el banco de españa

si kutxabank tiene que cumplir o no los ratios de solvencia que se exige a la banca

y luego le aplicamos la consecuencia

hay dos el caso de bankia y el de chipre a lo mejor alguien inventa una tercera pero de momento son las conocidas

y evidentemente nosotros estamos a favor de que cumpla los criterios de solvencia señor prieto dice usted que la ley vasca se hizo de forma apresurada

tarde incumpliendo las obligaciones de cuando tenía que haber estado aprobada porque señor prieto el modelo que tenemos es el que se diseñó desde el gobierno

y hubo que hacer una ley vasca para adaptarnos a la legislación del señor rodríguez zapatero ese es el modelo que tenemos vamos a ver aquí todos si nos acordamos de por qué estamos hoy aquí y de dónde venimos

si en esa ley

es porque nosotros dijimos vamos a regularlas porque todavía las cajas las van a obligar a desaparecer y si van a ser fundaciones privadas por lo menos

y eso es así y se hizo tarde no apresuradamente muy tarde incumpliendo todos los plazos obligatorios de adaptación de la legislación de las cajas y

que se mantenga vitalquiler pues si ya sabe que se mantiene por qué se niega usted a que se mantenga también

y que el control publico de las cajas se está perdiendo hasta donde yo sé a día de hoy siguen teniendo los mismos dueños que tenían antes

la que aprobó el partido socialista la que planteó el partido socialista a la que nos tuvimos que adaptar aquí en la ley vasca por eso había que adaptar la ley vasca

si hoy hay menos control público según usted será gracias al partido socialista porque nosotros aquí lo que hicimos era adaptarnos

señor damborenea usted no solamente se equivoca

se inventa los argumentos y escucha cosas que aquí no se han dicho y hágaselo mirar porque por un momento he pensado que usted estaba emulando aquella cosa que pasaba con las caras de belmez

ha utilizado argumentos que los ha puesto en mi boca y que en base a eso ha construido una contestación

pero en fin polvos calver que

bildu nos plantea que este parlamento se pronuncie si está de acuerdo con

a la obra social en las cajas vascas este es el planteamiento de la propuesta que luego ha sido

desde nuestro punto de vista con algunas cuestiones más concretas este es el planteamiento y este parlamento tiene que manifestarse a ese respecto yo puedo entender que usted tenga una escasa sensibilidad social y que usted venga aquí siempre de notario a decir es que las cosas son así y así y así

antes de entrar en este parlamento para qué entramos a este parlamento este parlamento tiene voluntad de cambiar las cosas este parlamento tiene voluntad de hacer debates

entra por la puerta porque aquí hay una propuesta para

porque recortar las dotaciones sociales es una política antisocial en una época de crisis más en una época de penuria económica más

muy mal muchísimo más este es el problema y

para apelar a la sensibilidad social y usted no tiene ninguna sensibilidad social es lo que viene a manifestar aquí y este es el problema y esta es la división

entre la derecha y la izquierda aunque usted cuando habla de izquierda habla de esa forma tan despectiva como si

no yo no hablo despectivamente de eso señor semper yo

confronto porque son ustedes rematadamente malos y obviamente hay que confrontar pero

en una sociedad plural en la que todo el mundo no puede ser perfecto y tiene que haber un poco de todo y entonces también están ustedes

estamos discutiendo lo que estamos discutiendo que es la obra social y la obra social de las cajas

como partido popular que tiene para la ciudadanía vasca es que haya hachazos y hachazos a la política social como consecuencia de una política bancaria que está demostrando que es nefasta que no arregla ningún problema

los costes de la recuperación bancaria y los desaguisados de los bancos si usted toda ambición política es seguir la estela de esa política bancaria pues ese es el problema su falta de sensibilidad social a usted

no le preocupa la ciudadanía le preocupa el futuro de los bancos oiga mire los bancos son instrumentos al servicio de la ciudadanía no tienen por qué servir para otra cosa no son otra cosa

con esa función social y la hayan cambiado pero nosotros tenemos voluntad aquí sí desde la izquierda tenemos voluntad de cambiar de la política que tiene el sistema bancario porque queremos que haya una política social mayor este es el problema por lo tanto el recorte del gasto social señora gorospe

con esta crisis y con los beneficios que tiene hoy kutxabank con otra política bancaria se podrían destinar más recursos a la obra social a que

que sí pues eso ya la ha movido que sí se ha equivocado de la dirección pero eso

nosotros nos pronunciamos a favor de la política social favorable a los ciudadanos que haya más política social que haya más

aquí vitalquiler porque usted miente en eso en el año dos mil trece después de haber querido cargarse este programa lo han tenido que mantener por la presión que ha habido pero para el año dos mil catorce no se sabe qué va a ocurrir y para los nuevos posibles beneficiarios tampoco porque no se quiere dar cabida a nadie más y por eso lo hemos traído también a esta propuesta cambien un poquito y

para un parlamentario sea del color que sea saber que puede hacer algo por el conjunto de la ciudadanía debiera de ser un estímulo y también debiera de serlo para usted aunque parece que usted se fija solamente en una minoría

tranquilo señor prieto porque en euskadi contamos con la fortuna de tener las cajas

nosotros protegemos a todas y creemos que tenemos un privilegio por lo tanto puede estar usted tranquilo porque tenemos aquí una situación particularmente ventajosa

no porque populares está antes la enmienda bozkatu dezakegu

señorías hay muchas razones para hacer avanzar

conectar la escuela con la sociedad los niños y las niñas no deben sentir de ninguna de las maneras que entran en el túnel del tiempo

todo lo contrario y además lo deben hacer en pie de igualdad por lo tanto primera razón conectar la escuela con la sociedad con los valores de una sociedad con alta tecnología

la segunda sin duda es la enseñanza personalizada una aula con veinticinco alumnos recoge veinticinco destrezas diferentes

y las altas tecnologías las tecnologías permiten que cada niño se desarrolle a su velocidad de tal manera que el más rápido no se aburra ni el más lento sea esquinado la tercera sin duda es la extensión en la red una cuestión que nos importa que nos ha importado y que es objetivo fundamental

es extender también clasificar también los valores de la educación en el ciberespacio una cuestión también de importancia para nosotros y cómo no

técnica que nuestros alumnos y alumnas necesitan para tener una ventaja comparativa a la hora de acceder al mercado laboral estas como digo y otras son las razones para avanzar en eskola dos punto cero pero qué es eskola dos punto cero eskola bi puntu zero no son las tic para las tac

y las tac son las tecnologías de información y comunicación y son las tecnologías de aprendizaje y comunicación

es fundamentalmente un proceso de formación del profesorado a escala la formación del profesorado a gran escala empezó antes de llegar el equipamiento a la escuela y ha venido siguiendo fuera y dentro del aula porque pensamos y seguimos pensando

el profesor la profesora tiene que seguir en el puente de mando

es además producción de materiales digitales especialmente en euskera

puesto que en castellano y en inglés existen

por lo tanto es producción de materiales digitales qué más es

es haber pasado de aquella aula famosa de informática a la que se iba con un gran material pesado

al aula ligera al aula ya que tiene un espacio virtual

habita y aprende el alumnado por lo tanto eskola dos punto cero es un objetivo a seguir trabajando y yo me congratulo nos congratulamos creo que muchos ya

en este hemiciclo hoy porque hemos logrado conectar nuestras sensibilidades y hacer que efectivamente tengamos encima de la mesa una propuesta un acuerdo

importante que afirma creo que lo esencial en primer lugar que la escuela tiene que

a las necesidades de la sociedad vasca en cuanto a formación se refiere y viviendo en un mundo globalizado pues ha de atender al principio

valga la redundancia del proceso de la evolución que no sobrevive el más fuerte sino el que más capacidad tiene para adaptarse a los cambios en definitiva el más inteligente así que la enmienda

transaccional a la que hemos llegado aglutina esos principios en primer lugar la necesidad de que la escuela y la sociedad estén perfectamente conectadas

porque hay un proceso de modernización del sistema educativo en marcha

tecnologías de información y comunicación es eskola dos punto cero qué más dice la enmienda la enmienda pide al gobierno que eskola dos punto cero con las adaptaciones que resulten menester y que desde luego

y que refuerce la formación de los profesionales qué más dice la enmienda la enmienda persigue la evaluación del programa porque

en lo que es un sistema científico que evalúa que consigue resultados y que más tarde aplica esos resultados a la planificación

y por lo tanto finalmente concluye afirmando que se siga con lo que es la oferta de

actualizar eskola dos punto cero y proceder a una planificación que satisfaga las necesidades contemporáneas nada más

congratularnos por el acuerdo alcanzado y reiterar nuestro agradecimiento del grupo socialista a la cámara muchas gracias

muchas gracias señora presidenta y muy brevemente para explicar el respaldo del grupo popular a esta iniciativa el partido popular

dos punto cero supone y supuso desde el principio una apuesta por la transformación tecnológica y por la modernización del sistema educativo y

nosotros creemos que se deben seguir extendiendo esas herramientas informáticas digitales al conjunto

en tratar de extenderlo a todos los centros sostenidos con fondos públicos

centros que en este momento pueden estar más retrasados en la implantación de nuevas tecnologías supone todo ello un esfuerzo importante

pero el resto desde luego está en convertirlas

de herramientas sino sobre todo de cómo esas herramientas en instrumentos verdaderamente útiles para la adquisición del conocimiento como se ha dicho aquí pero sobre todo como una oportunidad para mejorar el aprendizaje un elemento para la modernización y sobre todo también un elemento para la implicación de los alumnos y también de los profesores y de los padres es preciso

se trata en este momento de poner empeño en la formación tecnológica y didáctica del profesorado necesitamos de verdad hacer un esfuerzo yo creo que mucho mayor en la formación de los profesores para que puedan sacar el mayor partido a esas herramientas a estos instrumentos

pueden poner a su disposición solo de esa manera se garantizará de verdad

y solo se podrá así conseguir que se puedan aprovechar todas las posibilidades que

dos punto cero se puedan aprovechar esas posibilidades

adecuándolo a las necesidades en este momento de los alumnos hablando también

de metodologías porque yo creo que esta es una apuesta que tiene que hablar necesariamente de

ellas y en lo que se refiere a la apuesta que tiene que hacer la escuela vasca y en esa línea estamos de acuerdo estamos de acuerdo

el planteamiento inicial del grupo socialista y desde luego también con el planteamiento que recoge de manera quizá más completa la enmienda de transacción